emango zaie transferitutako funtzioen ardura por otra parte fue esta misma cámara este parlamento vasco el que aprobó el día treinta de mayo de dos mil doce una moción consecuencia de una interpelación previa con arreglo al siguiente texto

el parlamento vasco considera que la gestión de archivos de titularidad estatal

debe ser competencia de las diputaciones forales por lo que insta al gobierno y a las tres diputaciones a poner en marcha los procedimientos legales y administrativos para su materialización garantizando la financiación para su desempeño llama la atención por tanto

de archivos de titularidad estatal pues bien es justamente esta voluntad

es esta voluntad subrayo la que este gobierno pretende materializar cabe recordar además que esta voluntad ha sido manifestada también por órganos de los propios territorios históricos

aprobó una moción sobre esta cuestión que decía lo siguiente las juntas generales de álava consideran que la gestión de archivos de titularidad estatal recientemente transferidos a la comunidad autónoma del país vasco debe ser competencia de las diputaciones forales

para su materialización garantizando la financiación para su desempeño borondate hori betetzeko

de la gestión de los archivos provinciales a la mayor brevedad posible atendiendo de este modo la voluntad de la comisión mixta de transferencias de las diputaciones forales y de esta cámara

en las respuestas que eso ya conocemos cuando se ha hecho ya lo he dicho yo la transferencia

que van a hacerlo nada más es decir porque no tiene ningún mandato imperativo de nadie

y cuando no no es decir y respecto a la transferencia al real decreto no dice en absoluto o

no dice en absoluto que se hará la transferencia lo que dice es que se podrá pero se lo transfiere a la comunidad a la administración de la comunidad autónoma mírese usted mire usted el real decreto al que ha hecho referencia

con arreglo a la legislación aplicable a sus territorios históricos podrán establecer los convenios de colaboración que estimen convenientes en las materias a que se refieren a esta podrán y si lo estiman conveniente y además

en esto pero mire a mí no me preocupa eso es decir usted no tiene obligación

que tiene unas influencias políticas y toma unas decisiones y yo procede la pregunta no se sorprenda porque le pregunto procede porque

a ceder una competencia que va a desmembrar que sabe que va a perder coordinación porque en la práctica es que en todas en museos en bibliotecas

no tiene usted ni capacidad de actuación ni las diputaciones cuentan con usted

va a hacer una competencia que ahora tiene ese gobierno por eso le digo la visión de país que usted desconoce claro que se aprobó aquí en este parlamento por

confederal del país como son el partido popular y ustedes el pnv no sé qué va a hacer bildu ahora

otra visión de país vamos a ver cuando discutamos esto qué visión tiene respecto a este asunto

porque lo que está claro es que estamos hablando de una competencia que tiene el gobierno de euskadi que es beneficioso que la tenga que permite una mayor operatividad y

en el borrador del decreto de transferencia no habla nada de coordinación ni de cláusulas en las que se pueda amarrar bien

ese asunto yo no digo que no haya una relación entre las administraciones todo lo contrario

y que se establezca por el bien de todos una mancomunidad

para recoger todas las sinergias y provocar actuaciones comunes de los archivos municipales de diputaciones del gobierno pero

o consorcios pero no cede la competencia la cede usted porque quiere cederla no porque tenga obligación en ningún texto legal por un motivo político que es el suyo pero que lleva a un desmembramiento de una competencia que puede ser importante para de una vez tener desde el gobierno vasco

una política cultural al menos en tema de archivos de forma completa y mejorar la administración el funcionamiento de la administración porque eso lleva además

incluso a la forma de elaborar documentos de manera común al aprovechamiento de todo eso

indica que no es real que usted no la puede controlar que las diputaciones hacen lo que tienen a bien esa es la práctica y usted pierde la competencia a cambio de nada

soy consciente lo que dice el decreto lo que dice el acuerdo mixto el acuerdo de la comisión mixta

cuando se aprobó el acuerdo de este parlamento no voy a volver a ese punto

es una solicitud del parlamento de las diputaciones y de las juntas generales

bere kabuz egin zuen por eso es por lo que el partido nacionalista vasco presentó la moción a esta cámara y fue aprobada en la sesión parlamentaria del treinta de mayo dos mil doce

este gobierno actúa conforme a lo requerido procediendo a dar los pasos necesarios que posibiliten la transferencia de la gestión no de las competencias de la gestión de los archivos de titularidad estatal a los territorios históricos y ello obviamente mediante el debido diálogo y consenso con los mismos mi referencia al ministerio por supuesto se ha comunicado con el ministro de educación

en este asunto de forma coordinada además le diré que sinceramente

comunes que deberían corresponder al conjunto de euskadi si esto le preocupa yo creo que

de ley de los documentos y archivos del país vasco el objetivo principal de dicha ley es precisamente sentar las bases para la configuración de un sistema integrado como usted estaba

mediante la nueva ley se procederá a regular el sistema de archivos de euskadi así como sus integrantes y los órganos de gestión así mismo

y por supuesto el derecho de la ciudadanía de acceso a los documentos archivísticos sin duda las diputaciones forales así como los ayuntamientos están directamente implicados en la mencionada ley

en materia de archivos de su titularidad de este modo a través de la coordinación interinstitucional se pretende fortalecer el sistema nacional de archivos de euskadi por tanto no se trata de perder nada señor reyes al contrario se trata de llevar a cabo una gestión coordinada y eficaz de los archivos

con independencia del lugar en que estos estén ubicados eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

buenos días señora consejera el grupo socialista le hace una pregunta relativa al informe sobre la viabilidad jurídica de la oficialidad internacional de las selecciones vascas este informe aparece en los presupuestos de la comunidad autónoma con una partida superior a los veinte mil euros

nos gustaría que usted nos explicara qué de nuevo aporta este informe a la situación de la oficialidad o no de las selecciones vascas eskerrik asko

señora consejera el informe que el gobierno vasco ha pagado con una partida superior a veinte mil euros

es un informe que pretendía un objetivo un informe que no pretendía ningún tipo de contraste y que no dice nada nuevo de lo que ya sabíamos por mucho que usted diga que se ha desmontado un mito

porque realmente la selecciones vascas podrán competir siempre y cuando no exista una en el estado que ya represente selección española de fútbol como ya existe no puede haber una selección vasca de fútbol eso es lo que ha dicho los tribunales y si no léase la sentencia ahora

eso es lo que ha dicho los tribunales con el recurso que puso euskadi y con el recurso que pusieron las selecciones catalanas por lo tanto cuando hablemos de las sentencias hablemos en la globalidad del tema y a mí me parece que llegado a este punto

me parece en fin un tanto irresponsable y osado con todos los problemas que tiene el país vasco y sobre todo el departamento que usted dirige y le diré más

hablar que la oficialidad de las selecciones vascas es una de las reivindicaciones de los ciudadanos vascos pues una vez más

creo que no es una reivindicación en masa de los vascos la necesidad o la demanda de que exista una selección de fútbol de baloncesto o de lo que ustedes quieran hablar y unir la oficialidad de las selecciones vascas a la convivencia democrática de un país me parece una vez más intentar ideologizar el tema que es a lo que ustedes se encargan en lo que tiene que ver con esto porque ustedes de esto hablan en los micrófonos

no llevan este tema para que de verdad se trate y de verdad se pueda cambiar la ley estatal que marca esto y esto es demagogia

cuando intentan unir la identidad en este caso al deporte por qué pues mire en opinión de los socialistas vascos ustedes en este tema como en otros tienen un complejo brutal respecto a esta bancada y están en la lucha de a ver quién representa más la identidad vasca el sentimiento vasco o no sé qué por intentar demostrar a un sector de la población que ustedes creen que se les escapa electoralmente para ver si así podemos

el tema de la oficialidad de las selecciones vascas es más serio de lo que ustedes creen esto está ideologizado y politizado desde el minuto uno

a algunos de la preocupación o no de que exista una selección vasca del deporte que ustedes estimen pero aquí hay dos recursos cataluña y euskadi y los tribunales han hablado

existirán selecciones oficiales vascas o catalanas siempre y cuando no exista en el estado español

seamos serios utilicemos el dinero de los impuestos de los ciudadanos vascos para los que hay que utilizarlo y cuando encarguemos informes

para que los papeles tengan un valor añadido esto es una tomadura de pelo porque el pnv aparte

poco más han hecho tienen representantes políticos en el congreso de los diputados sean valientes y presenten proposiciones de modificación de ley para que la realidad sea así y tengan menos complejos

el informe realizado tenía el objeto de detallar la viabilidad de la representación internacional del deporte federado vasco de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente

con todo su discurso para ello se ha realizado un análisis jurídico integral sin precedentes sobre la viabilidad de dicha representación internacional por parte de las propias federaciones deportivas dicho análisis requería precisas por una parte si dicha representación sería posible conforme al ordenamiento jurídico estatal y autonómico vigente

que son principalmente las que organizan y reglamentan las competiciones internacionales permitirían tal representación como consecuencia de este análisis integral cabe subrayar las siguientes aportaciones del citado informe que creo que era lo que le interesaba

que delimita los contornos de la actuación futura y que permite aportar una innovación jurídica relevante que hasta ahora no había sido examinada en ningún otro de los informes realizados previamente

que siguiendo y respetando estrictamente la legalidad interna e internacional debiera seguir una federación vasca que desease obtener el reconocimiento de su oficialidad internacional así mismo el informe dibuja los diferentes escenarios atendiendo a los estatutos internos de cada una de las respectivas federaciones internacionales

con el pronunciamiento jurídico del tribunal constitucional antes citado a diferencia de los anteriores este informe expone ejemplos concretos de procesos que han finalizado

bien mediante acuerdo interno en el seno de las federaciones internacionales en resumen el informe se enfoca desde una vertiente técnica aséptica y procesal analiza precedentes regulaciones internas e internacionales y atisba la dimensión europea comunitaria para actuar con seguridad jurídica

a la legalidad vigente nada que tenga que ver con todo lo que usted ha dicho eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

las leyes del gobierno de españa pero también la de cuidar de las personas de mi región y no hay nadie más vulnerable que aquel que tiene una enfermedad grave

no estamos de acuerdo con la implantación del copago en euskadi es una medida que no

ni el gobierno vasco en su conjunto es una medida innecesaria lo hemos dicho en innumerables ocasiones

consejero de salud y sin embargo lo vamos a aplicar en un período breve y en toda la comunidad hauek dira gure sailburuaren

no estamos de acuerdo con la implantación del copago en euskadi

que no apoya ni el departamento de salud ni el gobierno vasco en su conjunto es una medida innecesaria lo hemos dicho en innumerables ocasiones eso es lo que dice el consejero de salud hitz horiek berriro gogoratzen baditugu

yo entiendo que estas cosas pasen y de vez en cuando cuando se caiga del orden del día una interpelación afortunadamente en este parlamento no demasiado habitual

la hizo el dieciséis de enero han pasado cinco meses y la verdad es que me enorgullezco de que gestionando un departamento difícil no haya encontrado otra cosa que preguntarme hoy pero bueno se la voy a contestar

aunque creo que está contestada por la propia realidad quiero decir que resulta un tanto anacrónico responderle cuál son nuestras intenciones que es lo que usted pregunta

sino a los hechos y a las actuaciones que durante este tiempo hemos llevado a cabo y de las que supongo tiene usted constancia

y lo primero que debo señalar porque esr un hecho constatable es que ha sido precisamente la firme oposición del gobierno

a esta medida que calificamos de innecesaria y lo mantenemos impuesta por el gobierno de españa

haya sido la última comunidad autónoma de todo el estado en implantarla

no supone que renunciemos a mantener el recurso contra el real decreto dieciséis barra dos mil doce puesto en la anterior legislatura decreto con el que el gobierno del estado forzó el cumplimiento del copago ni tampoco que abandonemos política y jurídica contra el copago de farmacia hospitalaria que no hemos instaurado pero mientras se resuelven los contenciosos jurídicos ya lo dijimos

sino que hemos puesto en marcha los medios a nuestro alcance para que el copago

se logró retrasar pero que finalmente se ha impuesto se aplique del modo menos perjudicial posible para los ciudadanos y ciudadanas para las farmacias y para los trabajadores y trabajadoras de la administración

a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas ya que usted a eludido en su interpelación aunque luego lo ha omitido desde la tribuna a la perspectiva comparativa con el entorno

por persona y mes que le corresponde no tiene que adelantar más dinero

deja de pagar cuando llega a esa cifra máxima pero además aquí en euskadi y solo en euskadi hemos hecho frente al copago también a través de otro cauce

hemos sido capaces de articular me refiero a las ayudas económicas dirigidas a los colectivos más vulnerables pensionistas con rentas bajas personas desempleadas etcétera para que puedan mantener sus tratamientos médicos

no hay ningún baile de cifras sino simplemente

oportuno pedir las ayudas en su libertad individual ayudas que también anunciamos

una realidad ayudas para las que presupuestamos una dotación de dieciocho millónes de euros ampliables en el presupuesto de este ejercicio que cubrían el cien por ciento de lo aportado por las personas que tenían derecho y para las que hemos recibido todavía

y que comenzaremos a abonar el próximo mes ayudas que vienen a compensar no solo económicamente sino fundamentalmente en términos de equidad una medida como el copago insisto injusta ineficaz

más desfavorecidas económicamente y para las que más esfuerzo

a los gastos farmacéuticos ocasionados por su enfermedad

porque además hemos distribuido folletos y carteles informativos por los centros sanitarios así pues señoría frente al copago lo que ha hecho euskadi su gobierno

el político el social el económico el legal y el ético y en cada uno de esos ámbitos con la máxima intensidad convicción

como lo demuestran no ya las intenciones que usted requería sino los hechos y la realidad que le acabo de describir este departamento y este gobierno

erantzun si le va a hacer frente al copago o no y esa es la pregunta que tiene que responder

la medida que ha implementado para un sector de la sociedad eso es lo que tiene que hacer

ubera andrea me ha parecido entenderle que me decía que lo iba a traer permanentemente y me ha parecido que no me ha contestado que la interpelación es del dieciséis de enero

vamos a decir peculiar de entender el término permanentemente

que es otros seis meses se lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir

pero la realidad es la que es nosotros hemos hecho frente al copago con hechos señora ubera le gustará más o menos con hechos y no hemos retirado el copago a todos no no hemos retirado el copago a las rentas por encima de cien mil euros no lo hemos hecho de forma muy consciente no no

lo hemos hecho de forma muy consciente y además creemos que lo hemos hecho bien mire

en implantar el copago impuesto por el estado gracias al recurso que se puso la legislatura anterior y a la firme oposición del gobierno

lo hemos hecho de la forma menos perjudicial posible para todos los actores que participan en el copago farmacéutico a día de hoy solo en euskadi se ha logrado implementar medidas de compensación económica y en términos de equidad las ayudas económicas dirigidas a los colectivos más vulnerables

es un hecho como la copa de un pino sin olvidar que mantenemos nuestra batalla en los tribunales porque no vamos a tirar la toalla

desde el primer momento hemos considerado injusta e ineficaz

en todos los frentes y sustentada por lo dicho pero sobre todo por lo hecho sail honek gobernu honek

ubera andrea el proyecto del hospital de eibar es conocido y está en marcha

y usted y su grupo pueden estar tranquilos porque hay proyecto sanitario se trabajó en este proyecto en la legislatura pasada y como es nuestra obligación en esta legislatura

de los vecinos y vecinas de la comarca debabarrena para poder dar la respuesta más adecuada a sus necesidades ez balego proiekturik ez genuke ospitale bat

que la diputación foral de gipuzkoa nos la ha trasladado de una forma un tanto confusa se trata de un documento breve que no está firmado ni por la directora ni por el diputado ni tampoco va dirigido a nadie en concreto y debo decirle que posteriormente

se ha vuelto a dirigir al departamento al respecto pero al margen de estas consideraciones

esa propuesta que está en línea con la experiencia que ya tenemos en marcha

que a día de hoy atiende casos sociosanitarios no es por tanto una propuesta novedosa aunque es cierto que establecería dos polos sociosanitarios en gipuzkoa cuestión que nos parece valorable

donde participan gobierno vasco las tres diputaciones y los ayuntamientos a través de eudel ha presentado las nuevas líneas estratégicas sociosanitarias para euskadi con el objetivo de avanzar eficazmente en esta materia y hacerlo al servicio de las personas y con equidad en el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de euskadi le puedo garantizar que el entendimiento de las instituciones en este consejo vasco

está siendo hasta la fecha francamente bueno pero dicho esto

justifican un nuevo recurso con el número de camas que ustedes plantean que nos ha parecido elevado o por el contrario tendríamos una gran cantidad de camas sin ocupar por falta de solicitudes arlo

nosotros no sé si somos capaces de hacer un proyecto o no pero llevamos treinta y uno años junto con el partido socialista creando osakidetza ya era hora de que vinieran ustedes a proponer algo en el ámbito

bienvenida ya le he dicho que nuestro objetivo es dar la respuesta a las necesidades de las personas y en estos momentos la propuesta que a usted le parecerá muy clara pues no nos parece que está suficientemente trabajada pero no se exalte no estamos en absoluto cerrados a que sin alterar los plazos

con el que nos hemos comprometido y sin alterar la prestación sanitaria prevista que eibar necesita